está el pensamiento del partido nacionalista vasco a este respecto desde

un acuerdo abierto un acuerdo para el siglo veintiuno la salida de la crisis avanzando en un modelo socioeconómico propio más soberanía y autogobierno con concreciones

con la actualización de los derechos históricos y la institucionalización del derecho a decidir los cinco compromisos para un nuevo tiempo de convivencia

y los compromisos ya concretados este el pensamiento del partido nacionalista vasco

ha elaborado y ya conocemos de primera mano todavía no me ha dado tiempo a leer el documento de la vía vasca pero ni en el programa electoral

ni sobre el derecho a decidir ni nada parecido yo entiendo que

pero de esto no hay nada escrito hasta al parecer esta semana que no sé si por necesidades de guión obligados

el denominado proyecto de la vía vasca irakurriko dugu pero hay otros que ni siquiera se atreven a decir que el pueblo vasco exista es

sistemáticamente la intervención de patxi lópez califica lo nuestro de entelequia

habla de derechos de los ciudadanos no se le escapa ni por equivocación

habla del pueblo vasco euskal herria como expresión de su nacionalidad y la adicional del estatuto dice que la aceptación de ese estatuto no significa que el pueblo vasco no ya los territorios históricos sino el pueblo vasco renuncie a los derechos que le pudieran corresponder usted refúgiese en conceptos más o menos

evanescente sí porque se escapa sí nos ha anunciado toda una cartera todo un guión de incluso hasta modificaciones del texto constitucional al parecer este periplo electoral le va a llevar a usted a ordenar territorialmente el estado

podemos hablar de soberanía vamos a hablar de independencia de las modificaciones constitucionales si es para todo eso adelante

o no es el momento señor sémper

es el momento y usted me replica diciendo ya fue el momento

este parlamento o fue otra cámara la que incluso negó la posibilidad del diálogo el que se abriera un proceso negociador

dice que este país tiene el futuro de euskadi está garantizado y tiene un gran futuro estoy absolutamente de acuerdo no creo que vaya a pasar

políticas el futuro de euskadi está asegurado iruzurrik ez eh bildu

zuek ekarritako dokumentua da eta bigarrenak y es el referido a la famosa legalidad que para ustedes prescribe todo pero para mí no tanto

en el capítulo sobre mecanismos que permitan a la ciudadanía vasca adoptar libre y democráticamente decisiones entorno a su futuro político institucional en la referencia al a legalidad dice

de cualquier tipo de violencia y coacción siguiendo las normas y procedimientos legales y se marcan las normas y procedimientos legales diciendo

que dichos procedimientos legales se refieren a los vigentes en cada momento pudiendo ser modificados en el futuro

una limitación a la voluntad popular sino garantía de su ejercicio egibar jauna amaitzen joan mesedez no impedimento

que dice proclamar que la actualización y profundización en el autogobierno vasco a través de una reforma del marco jurídico que responda a las aspiraciones actuales

supone para la sociedad vasca un derecho en la búsqueda de un marco válido y un nuevo intento legítimo un nuevo intento legítimo

para superar los problemas y alcanzar una regulación adecuada a su normalización democrática a través de los instrumentos normativos y de participación que resulten de aplicación quiere decir esto que negar impedir la expresión o la evolución democrática

uno puede retrasar no es el camino el impedir

democráticas de los pueblos sea el catalán o sea el vasco y esa oportunidad

a participar sin prejuicios pero sí tenemos posiciones

y a usted no se le escapa ni por equivocación la palabra ciudadano y es muy curioso cuando su gobierno dice que lo primero son las personas

yo no tengo ningún inconveniente en reconocer y hablar del pueblo vasco pero el pueblo vasco está constituido por ciudadanos y ciudadanas libres e iguales no sé si usted está pensando en lo mismo sí porque

nunca lo de los ciudadanos que hasta cuando a hablado de una de las cuestiones que hacen que este sea el momento

tiene una subdimensión política claro política y social y económica y dice la paz de los pueblos

cuando aquí la banda terrorista eta asesinaba a un socialista a un popular a un empresario o a un nacionalista a un guardia civil era un pueblo el que estaba matando a otro pueblo

era una persona que en nombre del pueblo como salvapatrias mataba a otra persona

por lo tanto qué es esto de la paz entre los pueblos aquí lo que

entre los ciudadanos y la concordia entre los ciudadanos por lo tanto utilice de vez en cuando más el concepto de ciudadano que efectivamente

fue cuando dejamos de ser súbditos y empezamos a tener derechos y libertades

libres ciudadanía sociedad vasca eso es lo que tiene que conformar la voluntad del pueblo vasco

cuando décimos que revisamos nuestro entramado avanzar o retroceder y lo he planteado en dos

mejorar lo que tenemos aquí esto no es un folio en blanco como dijo alguno de su partido no aquí estamos viviendo

capacidad de autogobierno enorme convivencia entre diferentes y pacto entre distintos

si uno mejora mejora y garantiza el autogobierno

de los distintos y refuerza los pactos entre diferentes no lo contrario por eso es una de las condiciones debiera de ser tener mayor consenso que el que tuvo el estatuto

en cuanto a lo que significa de adaptarnos a la realidad y le he puesto algunos ejemplos la soberanía no es lo que era hay

compartidos en los que vivimos y hay decisiones que adoptamos aquí y otras en madrid y otras en bruselas y demasiadas a veces en berlín

y en cuanto más ámbitos de decisión participemos sin aislarnos más libres seremos mayor capacidad de influencia tendremos

contra soberanía exclusiva y excluyente un mundo que está derribando fronteras o

es que vivimos en un mundo en el que lo he dicho antes la economía está

pasa por encima de las fronteras la información

para las personas oiga no esto no es adaptarse a la nueva realidad lo que tenemos que hacer es ver cómo

definimos un nuevo modelo institucional político territorial como quiera llamarlo que sea capaz

sino de intentar participar en su gobernanza porque

ha puesto una serie de ejemplo algunos por cierto ya lo hacemos no entro en lo de los símbolos nacionales que eso me preocupa bastante cada vez que se habla de estas cuestiones

una política propia en el conjunto de europa y yo apuesto por una fiscalidad común europea

económica común en toda europa y por una política social común en toda europa porque yo quiero construir un continente yo quiero construir un continente que garantice mi capacidad de decidir por eso digo

usted está cerrando su propuesta en la exclusividad y en la exclusión de su capacidad yo la estoy abriendo y además les pediría a todos ábranse al mundo tal y como es

tenemos nuestra singularidad y es fundamental tendremos nuestra capacidad de decisión

tenemos que ser capaces de abrirnos y de participar con otro modelo sin fronteras sin exclusiones sin exclusividades en lo que se está construyendo

sí señora presidenta gracias

son muy claros es difícil llegar a un entendimiento con ellos porque viven en otro plano

apuesta por otro modelo completamente diferente del que tenemos

que tiene su espejo en venezuela en cuba en ese tipo de regímenes

pero ustedes sí tienen capacidad para ser más claros

para evolucionar con los tiempos sé que lo están intentando sé que lo han hecho berbotsa sé que hacen el esfuerzo

ha habido al menos tímidos intentos para hacerlo pero aún les queda miren se les desmorona el mundo

y una razón de ser en política que era la consecución de la independencia de euskal herria ese mundo se desmorona porque los estados nación los tradicionales

porque las propias demandas ciudadanas cambian y evolucionan porque hay la incorporación de una nueva generación que busca otras respuestas que ya no le valen las viejas respuestas tradicionales y que están reclamando cosas nuevas diferentes adaptadas a los tiempos

explicar de una manera sencilla ni con los conceptos tradicionales de izquierda ni derecha ni con los conceptos tradicionales de independencia soberanía

y ustedes no han sido capaces el imaginario nacionalista

y nos quieren arrastrar a todos a debates viejos y caducos que es muy legítimo que lo hagan pero no vamos a permitirlo porque el centro del debate

no es un pueblo porque en euskadi hay pueblos hay muchas identidades

y pretender homogeneizarlo es un gravísimo error aparte de un absurdo

persisten a base de excluir a los que no aceptan su concepción del pueblo vasco persisten en excluirnos de la categoría de vascos verdaderos

por eso la plaza pública ese el lugar en el que la civilidad en el que las instituciones legislan para que los ciudadanos en la plaza pública se puedan desarrollar

con plenos derechos y obligaciones eso es de lo que se trata y eso es lo que articulamos las sociedades modernas en torno a leyes

en torno a estatutos de autonomía como es el que tenemos que consiguió por primera vez en nuestra historia articular un marco de convivencia en el que todos desde la renuncia pero también desde pequeñas satisfacciones éramos capaces de convivir en la plaza pública y a usted nadie le impide vivir su vasquidad de la manera que crea oportuno porque eso se lo garantiza la legislación y la ley

cotas de expresión de lo vasco inéditas en nuestra historia insisto nunca antes euskadi tuvo entidad política como la tuvo

nunca existía una entidad política que era gipuzkoa

entidades políticas diferenciadas con regímenes en este caso forales diferenciados particulares y peculiares cada uno y es a partir del año mil novecientos setenta y nueve cuando de conforma políticamente cuando se da cuerpo político a una realidad euskadi e insisto se hace a través de renuncias y de encuentros y esa plaza pública que constituye el estatuto de autonomía es la que tenemos que preservar en la que todos independientemente de cómo sintamos

independientemente de cómo demos contenido a ese concepto a mi juicio viejo

de pueblo vasco podemos convivir en esta misma tierra

como le decía antes es muy grande pero es cada vez más pequeño y más cercano que se lo pregunten a nuestra empresas que se lo pregunten a nuestros empresarios a nuestros emprendedores

y que necesita certezas y fortalezas no necesita más broncas y más líos yo espero insisto que hayan aprendido

de aportar algo de cordura de sensatez y de reformas por qué no si son necesarias

guk gaur esan dugu hemos dicho anteriormente que nuestra intención era venir a abrir una puerta al futuro y nos vamos un poco con la sensación de que algunos se han empeñado en abrir una ventana que solo mire al pasado gaur zuek sinatu duzuena

una ponencia específica sobre autogobierno que evalúe sus logros y el estado actual del desarrollo estatutario y que de acuerdo con las normas y procedimientos legales y desde el máximo consenso posible

hoy mismo koldo mediavilla el responsable

en este asunto que ustedes se sienten más cerca del pse

esan ezazue azaldu ezazue hori horiek los que están en esa bancada y los que están en aquella se están poniendo de acuerdo

para que el tribunal constitucional pueda cortar toda posibilidad de una reforma estatutaria que contenga el derecho a decidir

con ese partido lo habéis acordado el poner en marcha esta ponencia

señor sémper lo que se está desmoronando es el estado español el estado español es lo que se desmorona fundamentalmente porque

la supuesta reforma democrática que no lo fue tal ya no aguanta más ha dado de sí treinta y cinco años ya no aguanta más catalanes y catalanas vascos y vascas

queremos irnos nuestra ansia de soberanía no ha sido satisfecha por aquel marco

que nos dieron con el ruido de los sables por detrás por lo que pudiera pasar teniendo en cuenta todo ello nos queremos ir qué problema hay qué problema hay en que vascos y vascas podamos decidir libre y democráticamente nuestro futuro qué problema tienen ustedes con la democracia

con el estado español con el francés con el continente europeo con el mundo con la galaxia con quien quiera usted

gracias presidenta yo insisto en lo que se planteaba en la justificación de la iniciativa original es decir el partido nacionalista vasco lo que viene a decir es que

españa tiene un grave problema de configuración del estado a partir de ahí lo que propone el partido nacionalista vasco no son medidas concretas para hacer de ese estado un estado viable igualitario eficaz o eficiente qué es lo que propone el partido nacionalista vasco evidentemente lo que propone es una cuyo objetivo fundamental es separarnos del resto de españa y sacarnos de europa creo que es evidente que es así el propio programa político del partido nacionalista vasco así lo recoge este es por lo tanto el objetivo pero en todo caso

ustedes y ustedes son los que proponen la ponencia y son ustedes los que tenían que habernos explicado a nosotros y al conjunto de los ciudadanos qué es lo que pretenden pero desde ya desde antes de la votación qué proponen exactamente cuál es su objetivo qué pasos pretenden dar no ya tanto qué van a dar

qué mayorías aspiran a obtener qué reforma estatutaria plantean

esto es lo que se tenía que haber explicado o en el caso del partido socialista qué nuevo modelo

de nuevo modelo tenían que haber explicado perfectamente y con claridad

para euskadi pero no solamente eso tendrían que haber propuesto también cómo encaja esa euskadi que ustedes plantean dentro del estado parte y tenían que haber explicado que modelo de estado defienden si defienden un estado federal si defienden un estado federal simétrico o asimétrico

lo que se tenía que haber explicado es decir no basta con decir que hay que actualizar el autogobierno sino explicar para qué y por qué y cómo casa

de españa y no solamente en el conjunto de españa sino en el conjunto de europa porque efectivamente ese es el futuro el futuro no puede ser levantar fronteras derribarlas ese es el futuro que tenemos delante nuestro que haya menos fronteras derribar las fronteras que existen no levantar nuevas

recordarles nuevamente cuáles son los límites no solamente los límites legales los límites legales

democráticos y los límites de los derechos ciudadanos esos son los límites nosotros tenemos nuestra propia enmienda creo que es la mejor vía para garantizar más igualdad y más libertad

estos son los cambios que deberían acometerse más que plantear

o cosa parecida creo que se plantean las propuestas que son necesarias para que al fin y al cabo todos podamos vivir mejor en euskadi en españa